desde elkarrekin podemos traemos una nueva iniciativa para afrontar las desigualdades de mujeres y hombres y erradicar las violencias machistas y otra vez más celebramos el acuerdo unánime que hemos alcanzado

pp nos consta que estaba bastante cercana al acuerdo e interesada con la propuesta que hoy presentamos aquí en el día de hoy

como sabemos la desigualdad es el pilar que sostienen las violencias machistas y como no podría ser de otra manera

existe una brecha de género y también se reproducen violencias

especial preocupación por la incidencia que pueden tener las desigualdades y las violencias machistas en la etapa adolescente pues las redes sociales son una herramientas de comunicación que está especialmente presente en la etapa adolescente y por lo tanto debemos tenerlas muy en cuenta a la hora de

esta iniciativa tiene como fin último contribuir a que las personas adolescentes y jóvenes puedan hacer proyectos educativos profesionales y de vida

en este parlamento compareció hace tiempo estíbaliz linares docente investigadora y doctora para presentarnos su investigación el iceberg

en euskadi en esta investigación se confirmaba que las redes sociales también están atravesadas por el machismo y en ellas se reproducen estereotipos roles prejuicios discriminación y violencias por motivos de género las realidades machistas digitales se manifiestan en forma de violencias machistas como es el ciberacoso o el cibercontrol

de la delegación del gobierno para la violencia de género realizada en dos mil catorce

adolescentes y jóvenes del estado español entre doce y veinticuatro años les habían tratado de controlar a través del teléfono móvil y el veinte por ciento había comprobado como utilizaban sus contraseñas dadas por confianza a sus parejas chicos

a un seis por ciento les habían suplantado la identidad utilizando esas contraseñas dadas y a un cuatro coma tres le habían difundido mensajes y fotos sin su consentimiento o a través del móvil casi un doce por ciento de estas jóvenes habían sido intimidadas por mensajería móvil

y también además se manifiestan a través de lo que se conocen como segunda

salta a la vista que los sectores de la informática y la tecnología están fuertemente masculinizados porque las y los adolescentes eligen estudios y perfilan profesión

por estereotipos y mandatos de género todavía existe

profesión por todo ello presentamos una propuesta con medidas para intervenir en las realidades machistas digitales son medidas para

por motivos de género desde elkarrekin podemos queremos avanzar hacia una mayor igualdad de mujeres y hombres en todos los estamentos de las tic y la tecnología

y sobre todo queremos que nuestras adolescentes y jóvenes puedan hacer proyectos educativos profesionales y de vida libres de estereotipos prejuicios y violencias por motivos de género brevemente voy a compartir la síntesis de los puntos que hemos acordado entre

y que lo más seguro es que sea aprobado también por el partido popular

desarrollamos tres puntos uno es desarrollar una línea de sensibilización en el segundo plan de coeducación sobre las realidades machistas digitales entre las que se encuentran el ciberacoso sexual

dos formación para el profesorado no universitario sobre esta realidad y cómo abordarla en los centros educativos y tres a través del programa beldur barik trabajar con las propias adolescentes para que

y hay dos puntos más que son para afrontar las brechas digitales que uno de ellos es sensibilizar e informar en los ámbitos de la educación de los sectores

y privados sobre la existencia de la segunda y tercera brecha digital de género y por último promover

adolescentes y jóvenes a sectores informáticos y tecnologías

para el desarrollo de los sectores informáticos y de tecnología solo queda decir que muchas gracias a todas las compañeras que han estado

negociando hasta el último momento para llegar a un acuerdo en un tema tan interesante y tan importante como es este así que gracias de nuevo por el trabajo y por la buena disposición para alcanzar un acuerdo una vez más creo que tenemos que estar de enhorabuena porque seguimos facilitando con esta iniciativa por parte de elkarrekin podemos y por la suma del resto de partidos
acuerdos para la igualdad y erradicar las violencias machistas eskerrik asko eskerrik asko arana

que este es un fenómeno creciente que sin duda hay que atajar sobre todo por el papel de difusión que juegan las redes sociales las nuevas tecnologías en el mundo actual afecta sobre todo a los adolescentes según los estudios que se han hecho

de las personas que utilizan las redes sociales que son sobre todo jóvenes

hablamos de actuaciones en tres ámbitos en el ámbito de la prevención de la detección y ya de la actuación concreta

protocolos concretos de intervención y también guías de orientación para las familias de las víctimas adolescentes estamos hablando sobre todo de incidir en tres ámbitos concretos el psicológico el jurídico y el tic técnico

de la violencia de género que se puede producir a través de las redes sociales se pueden multiplicar los efectos de esta violencia por la propia viralidad de las redes

los agresores también se pueden esconder en un anonimato

en ciertas ocasiones la impunidad y es algo que también hay que tener en cuenta la propia indefensión de la víctima

maltratadores por el propio funcionamiento y perfil de las redes sociales la continuidad en el tiempo de estas actuaciones con los efectos psicológicos que pueden conllevar en las personas que las sufren

de las redes hay que tenerla en cuenta para nosotros también es muy importante y de alguna forma nos hubiera

en esta cuestión pero como he dicho al principio también por falta de tiempo porque pensábamos que se anunciaba más tarde a lo largo de la mañana

pues bueno no hemos podido abordarlo pues quizá con el detalle

gustado pero sí que quería recalcar también la importancia del ámbito educativo la educación en valores de alguna forma sí que queda recogida como ha señalado la portavoz de podemos sobre todo educación en valores lo que es la responsabilidad el respeto la tolerancia

para también poder actuar en el ámbito de la prevención en las redes sociales por lo tanto creemos que es un avance el acuerdo alcanzado y en ese sentido
pues lo votaremos a favor besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

y efectivamente la evolución respecto al mismo es conocida por todos hoy hablamos del tema de las redes sociales fundamentalmente en la edad de la adolescencia

pero mucho más en algunas edades como es la adolescencia y la juventud de nuestra sociedad refleja un espacio más de la violencia machista que desde luego la administración se encarga de resolver hace falta educación educación como decía la señora etxebarrieta por parte de los profesores pero también

hace falta información porque es verdad que forma parte del día a día pero hay un gran desconocimiento sobre las consecuencias

y por supuesto hace falta que la administración ponga en marcha mecanismos de control el acuerdo alcanzado parece que de forma unánime como decía la señora

un acuerdo y un compromiso por parte de todos los grupos parlamentarios cada vez que debatimos algo relacionado con la violencia machista somos capaces de acordar porque refleja el compromiso y la preocupación de todos los que formamos parte de esta cámara el gobierno vasco ya está trabajando en este asunto desde hace tiempo

siempre implementan las acciones a realizar teniendo como objetivo erradicar en este caso la violencia machista la enmienda alcanzada recoge la necesidad de seguir trabajando en esta realidad y la firma de la misma recoge como decía el compromiso y preocupación de quienes formamos parte de este parlamento la tesis de estibaliz linares a la que ya se han referido quienes me han precedido en el uso de la palabra

ya que se encuentran tantos espacios transformadores como sumamente machistas lo que quiere decir que las tecnologías por sí solas no aseguran un espacio

a seguir comprometiéndonos con la violencia machista y no olvidar que este tema no termina de evolucionar que cada día nos enfrentamos a nuevas formas de reflejarse

alegrarnos de que sea un acuerdo por unanimidad y reconocer el trabajo de la señora arana y su generosidad a la hora de ceder en algunos aspectos que ella consideraba importantes en aras
a que fuera aprobado por unanimidad nada más muchas gracias eskerrik asko

guztioi egun on euskadi tiene un problema con las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de aguas residuales

muchas infraestructuras de saneamiento que hacen que la calidad del agua de nuestros ríos y la calidad ecológica y la calidad del agua

una necesidad de infraestructuras y nos faltan los recursos económicos necesarios

a lo largo de toda esta legislatura y posiblemente de las anteriores han llegado a este parlamento a la comisión de medio ambiente

la depuradoras del alto nervión con el funcionamiento de la depuradora de agurain

etcétera etcétera las administraciones

infraestructuras son justo las instituciones que menos recursos tienen que son las administraciones locales

eso obliga a que otras administraciones en este caso el gobierno vasco hagan un esfuerzo por ayudar con sus recursos a estas otras administraciones y lo hacen a través de convenios

la cuestión es cómo se reparte ese dinero a quién llega y a quién no llega porque en un problema como este

más necesidades que recursos la cuestión es priorizar las inversiones eta kontua da nola ezartzen ditugun lehentasunak hemen

ikusita nuestro grupo preguntó

para repartir el dinero cómo hacía para organizar

el gobierno nos dijo en primer lugar que no existía una convocatoria pública que se atendían las necesidades en función de las peticiones

y nos dijo expresamente que era en función de criterios de oportunidad

esa es la manera con la que se reparte el presupuesto y con la que se firman los convenios criterios de oportunidad e idoneidad no los vamos a poner en cuestión pero sí queremos dejar de manifiesto

interpretables no voy a decir subjetivos pero al menos interpretables la oportunidad

y se nos dijo por parte del gobierno que era la fracción es decir el porcentaje más ajustado a los objetivos de ura

sospechamos cuáles pueden ser los objetivos de ura y que pueden ser los objetivos generales del país pero

se nos dijo por parte del gobierno que los criterios de ayuda procuraban ser homogéneos para los tres territorios pero sin embargo nuestro grupo

las cantidades asignadas a los diferentes convenios desde dos mil diez hasta dos mil dieciocho y ese criterio no nos cuadra y cuando menciona aquí que son los

dos mil diez a dos mil dieciocho dejo constancia de que este no es un problema de este gobierno y no es un problema de esta legislatura es un problema que arrastramos y que por lo tanto no

desde hace tiempo y es que con los convenios en la mano en los últimos ocho años bizkaia ha recibido sesenta millónes de euros gipuzkoa quince coma cinco y araba

y si quitamos cuarenta y nueve millónes que ha recibido busturia para su depuradora que es una cosa especial seguimos teniendo con que gipuzkoa ha tenido quince millónes de euros bizkaia ha tenido once y araba ha tenido ochocientos mil euros

los ríos y las masas de agua de araba las que peores

presentan a día de hoy con solo un veinticinco por ciento de las masas de agua en estado bueno y si miramos hacia los convenios suscritos pues vamos a ver otra vez una asimetría porque tenemos con que el consorcio de aguas bilbao bizkaia que posiblemente es el que más recursos ha recibido de once millónes de euros el consorcio de aguas de gipuzkoa ha recibido siete coma siete

y sin embargo txingudi trescientos mil euros y amvisa

y algunos como kantauriko urkidetza han recibido cero euros durante estos ocho años con esto vuelvo a decir vuelvo a reiterar no estoy poniendo de manifiesto una

deliberadamente desigualitaria permítanme la expresión lo que estoy poniendo de manifiesto es que en la medida que no hay criterios objetivos estamos

sea la evolución de los acontecimientos lo que nos lleve a dar respuestas en forma de parches y no una respuesta estructurada horrexegatik guk gaur

nuestra petición consideramos que es sensata que es razonable a evitar problemas que ya tenemos encima de la mesa y sobre todo que se dirige a organizar una gobernanza más transparente más propia del siglo veintiuno que
del siglo que ya hemos abandonado y por nuestra parte nada más gracias y espero que esta petición tenga el apoyo de los grupos eskerrik asko becerra jauna

habla de las ordenanzas locales reguladas del servicio de abastecimiento que tienen que venir

de una regulación o de un reglamento en marco de prestación de servicio en el que se regulan algunas cuestiones pero en ningún caso habla de

o cómo se accede a esa financiación que es lo que se pretende regular o

otra vez a todos pues señor otero el problema de la falta de acuerdo es la falta de reconocer las competencias de cada una de las instituciones e intentar

para que al final siempre sea ura la que acaba saliendo sí en auxilio y no se entiende el auxilio como calidad

se quiere plantear de forma peyorativa pero efectivamente sabemos cuáles son las competencias de los ayuntamientos y sabemos qué es lo que le corresponde a la agencia vasca del agua

a la hora de llegar a un acuerdo que es el motivo por el que no se ha podido firmar una enmienda transaccional aparte de otros temas que casi quedan fuera de esto

tiene como responsabilidad fundamental la planificación hidrológica la prevención de inundaciones y la conservación y restauración de las masas de agua sin embargo puede también ejercer y ejerce el papel de auxilio a los entes gestores del ciclo urbano del agua a los responsables del mismo

y saneamiento porque es verdad que a veces esto cuesta entenderlo pero siempre se quiere tirar de los presupuestos del mismo y todo ello lo realiza siempre en función de la disponibilidad

presupuestaria presupuestos que luego ustedes ni unos ni otros acaban apoyando nunca y por tanto ura acaba teniendo un presupuesto cada vez

es de destacar que en el año dos mil ocho el presupuesto destinado a inversiones de ura era de cincuenta y cinco coma tres millónes de euros en el año dos mil diez cuarenta coma ocho millónes de euros

sin moverse hay que aprobar los presupuestos también señor otero y hacer propuestas aparte de solo criticarlas

era una que es la que disponía ura mientras que se mantienen las demandas de auxilio que no dejan de llegar a lakua en inversiones no propias de la responsabilidad directa de la agencia en relación concreta a la proposición no de ley planteada por el señor becerra

que consideramos deben adoptarse en función del beneficio a obtener en términos de estado ecológico de las masas de agua en coherencia con la planificación hidrológica

sean aquellos que ofrezcan garantía suficiente de solvencia técnica y económica para llevar a cabo la gestión sostenible del ciclo urbano procediendo

amortización mantenimiento y recuperación de los costes del servicio y de las infraestructuras porque ustedes saben que esto no siempre pasa llega a veces la infraestructura y luego hay que mantener hay que seguir invirtiendo y hay que estar con los criterios técnicos por ejemplo

un ejemplo que todos conocerán conocerán bien la jerarquización realizada en el acuerdo marco al que se ha referido el señor otero

del agua en el año dos mil diecisiete para la financiación y ejecución de infraestructuras hidráulicas en el territorio de álava responde en congruencia con los objetivos de la planificación hidrológica a la necesidad de obtener con las primeras inversiones priorizadas el balance más favorable coste beneficio de la inversión pública se entiende como beneficio de corrección de las mayores deficiencias en estado ecológico de las masas de agua en relación con población afectada o atendida y que hacen necesaria su actuación

que se ha visto afectado por esto a la hora de realizar la jerarquización de un orden de prioridades que atendiera un análisis coste beneficio de las actuaciones contempladas en ese acuerdo marco referido

en la que tanto la población en riesgo como la evaluación de daños es más fácilmente cuantificable e incluso monetarizable en materia de satisfacción de garantía de abastecimiento y de estado ecológico no queda más remedio que adoptar valoraciones sustancialmente cualitativas

es el territorio histórico que en este asunto de las obras hidráulicas de las inversiones siempre está

entre comillas provinciano del asunto hay que reconocer que es de álava de lo que normalmente se habla

en la provincia más pequeña y eso también añade dificultades de gestión

dos mil dieciséis dos mil veintiséis realizado por la diputación firmante del acuerdo dicho plan identificó las actuaciones identificadas como necesarias destacando la especial importancia que adquiere el momento óptimo para la realización de cada actuación en el contexto de los presupuestos destinados a inversión por la diputación que expresa como limitadas

es recomendable acometer cada actuación el plan define una serie de criterios mediantes los cuales se valoran cada una de las actuaciones

la suma de la puntuación de todos los criterios que recibe cada actuación

de forma que las actuaciones con mayor relevancia serían las que se ejecutarían primero

y eso es conocido por todos qué porcentaje se tiene y así es como se ha hecho todos estos estudios

por todos es un buen ejemplo y bien reciente en la memoria de todos

atendiendo a criterios objetivos ni subjetivos

objetivos de coste beneficio en términos de estado ecológico de las masas de agua en coherencia con la planificación hidrológica y en relación siempre con la poblacion afectada pero además para una mayor transparencia y garantía de aplicación el gobierno vasco cree importante y así se proponía en la enmienda la realización de un reglamento

este reglamento fue sometido a consulta pública previa el pasado mes de mayo y el anteproyecto que ura ya ha elaborado está en estos momentos tratándose con los agentes implicados de los

por todo lo dicho hasta ahora creemos que efectivamente los fondos destinados por el gobierno vasco a través de la agencia vasca del agua ura auxiliar

deben aplicarse siempre teniendo en cuenta unos criterios concretos criterios que respondan a principios concretos pero sin olvidar quiénes son los competentes en este asunto asimismo estarán de acuerdo con las prioridades establecidas en los planes hidrológicos

y buscando optimizar el impacto de la inversión y su retorno social y ambiental pero no menos importante entre los criterios a tener en cuenta a la hora de establecer los objetivos para la necesario priorización ha de ser la adecuada amortización y mantenimiento porque

que es un municipio que va por la segunda depuradora y todos sabemos cuál ha sido el problema de la primera porque hay que tener capacidad técnica para ser capaces de mantener la infraestructura

velar porque todos los municipios vascos tengan agua en condiciones pero no nos olvidemos quiénes son los responsables del abastecimiento

es verdad que hay ayuntamientos que tienen dificultades para luego llevar a cabo determinadas actuaciones pero no nos olvidemos que la ley dice lo que dice y que además el dinero que se inyecta a veces en los ayuntamiento cuando se cobra por el servicio de aguas

en la red para que eso revierta en el bienestar de los ciudadanos y todos sabemos que no siempre se hace

la aplicación de estos criterios siempre teniendo en cuenta cuál es el objetivo principal que es que los ciudadanos vascos reciban el mejor servicio de aguas

creyendo que íbamos a ser capaces todos de llegar a un acuerdo termino como he empezado ceo que la dificultad ha sido más

no tener en cuenta de quiénes son las competencias porque yo creo que al final la preocupación de todos es la misma

gobierne quien gobierne y sea quien sea quien tenga que hacerlo es el criterio técnico la solvencia técnica ya veremos cuántos ayuntamientos se quedarían fuera de esos criterios que ustedes ponen por encima de todo lo demás por tanto decir

nos ponemos la medalla del municipalismo y tenemos en cuenta cuáles son las competencias que tiene cada institución y luego llega el debate foral de quienes entienden cuál es el papel de las diputaciones y luego queremos que el gobierno vasco esté como paraguas por encima de todo

pero debemos velar por el cumplimiento y las competencias siempre y no solo cuando parece interesarnos y también como terminé la semana pasada decir a las puertas de debatir el presupuesto y está muy bien aquí siempre

aumentando las partidas presupuestarias en este caso para las infraestructuras hidráulicas sobre todo en álava que es la provincia que más demandas ha tenido porque es verdad

pues acordémonos cuando vayamos a dar al botón el día de votar a favor o en contra que también esto está afectado y que

con las obras hidráulicas en cada una de las tres provincias y luego no olvidemos que somos un país muy pequeño con tres provincias que están organizadas

con el servicio del agua y como digo como alavesa digo que en mi provincia somos más de doscientos cincuenta entes gestores y eso dificulta mucho la hora de la gestión del agua pero acordémonos de quién tiene

posturas prefijadas y parece que aún no han decidido el sentido de su voto y además la dinámica de este debate hace que ustedes vayan a hablar después de nosotros con lo cual me voy a fajar al empeño de convencerla de que no vote a favor de la enmienda transaccional

no dejes que la realidad estropee una buena teoría eta teoria hau lehiaketa publikoarena gardentasunarena

es estéticamente impecable pero las dificultades técnicas

cuando se vaya a aplicar si es que se puede aplicar

concurso público donde los objetivos y los condicionantes son evaluables hay

cada proyecto o cada biblioteca tendrá el suyo dependiendo de su tamaño del nivel de eficiencia

talleres de lectura para mayores que hayan hecho en los últimos cinco años habrá una serie de criterios que sean fácilmente baremables cuantificables y finalmente

pues se puede hacer en parte podemos solicitó cuáles eran los criterios que ura utiliza para repartir los fondos de ayuda pública y

y también los de equilibrio territorial y digo especificar mucho más es complicado porque los distintos destinatarios son absolutamente

en álava como ha dicho la señora rojo trescientos cincuenta y siete entes que gestionan el ciclo integral del agua

son apenas una décima parte por cierto y aprovecho para tirarle de las orejas señor becerra siempre que hablamos de ura le suelta usted alguna pequeña

el referente que tenemos en bizkaia el que más se acerca

marco del agua que son las de autofinanciación del servicio de abastecimiento y saneamiento es decir que aquel que utilice el agua lo pague

casi todos los años reconocimientos de fuera de euskadi que tiene una solvencia técnica gigantesca yo que siempre aparece alguna crítica así

pues yo los quiero poner en valor al ente en sí y a sus trabajadores que sé de primera mano que son fenomenales más dificultades

hay después criterios distintos entre los distintos entes y esto cómo se evalúa por ejemplo el consorcio de carranza el consorcio de carranza mantiene tasas muy bajas

porque considera que si sube el precio del saneamiento por ejemplo el primer sector sufriría en una comarca

en un concurso público sin mediación de técnicos sin mediación de la opinión técnica

otra dificultad añadida la diversidad de los convenios

en algunas en muchas el ayuntamiento pone a disposición de ura las tierras en otras hay una por ejemplo en álava una diferenciación entre concejos

con sus competencias todo esto es imposible de baremar objetivamente fríamente y matemáticamente

en un posible concurso público y es que no hay nada más injusto que tratar a todos por igual por ejemplo si hablamos de abrir un concurso quién va a tener más capacidad técnica tuvimos en la comisión de medio ambiente por ejemplo al concejo de manzanos manzanos es un municipio que no sé si tendrá trescientos habitantes en fin pues la capacidad técnica que pueda tener

muy limitada quién va a tener mayores ventajas si lo que se quiere es hacer un recurso

de vestir mejor entre comillas vestir un proyecto técnico

o manzanos vamos a instaurar unos objetivos evaluables para qué para que funcione peor y después volvamos

que se vuelva a la mediación del criterio político de la discrecionalidad política que por cierto

de la representatividad que tenemos aquí todos y todas beraz pega guzti hauek ez ditu jartzen esateko

gracias señora presidenta señorías por empezar por el final señor arruabarrena creo que

tienen una larga trayectoria y mi criterio está perfectamente definido si tiene alguna duda vaya a la hemeroteca y repase

le agradezco su voluntad docente pero yo me voy a

datos medibles datos cuantificables y hacía una referencia al consorcio de aguas de bilbao como modelo si es un modelo de gestión por qué su partido presentó una enmienda a los presupuestos generales del estado

me puede dar luego el dato exacto porque usted lo tendrá por lo tanto

si ese es el modelo de obras hidráulicas ineficientes de los vertidos aquí han venido a esta cámara los vertidos de la red de aguas de bilbao

ese no es el modelo y hablando de consorcios a mí me sorprende que ura en su respuesta no haga referencia más que al consorcio de aguas de amvisa pero es que álava tiene muchos más consorcios de rioja alavesa de la llanada de

esa es la gestión diez años de ura y desconoce

por lo tanto qué vamos a esperar qué vamos a esperar de una administración que dice que es la responsable y no conoce los entes que tiene

de esto ustedes saben mucho sabe su gobierno y sabe su partido también nos pueden dar clases mire en el año mil novecientos noventa y cuatro fue transferida la competencia de aguas a la comunidad autónoma vasca y que de acuerdo a la ley de territorios históricos debería de haber recaído

señora rojo vamos a velar por las competencias ya

por lo tanto de aquellos barros pues estos lodos y de aquellos polvos estos lodos como quiera pero esa es

el mal inicio de esta gestión ahí recae el mayor error no sé si ustedes tuvieron algo en esta cuestión lo que debería haber sido una transferencia de funciones y servicios a las diputaciones forales fue una usurpación de competencias forales y el gobierno se dedicó en casos selectivos la discrecionalidad a prestar presupuesto económico a las diputaciones

con las administraciones locales auxilio no me gusta me

en materia de aguas de obras públicas de naturaleza hidráulica desde el traspaso de competencias a la aprobación de la ley de aguas transcurrieron doce años

en este caso eran las administraciones locales y las forales como entes colaboradores o cooperadores la ley de aguas lejos de corregir este incumplimiento sigue lesionando el régimen foral bordeando la ley de territorios históricos no respeta el estatuto de autonomía su ansia de poder les puede y son incapaces de comprender que hay cuestiones

como por ejemplo esta del agua tan próxima venía haciendo de manera habitual y con muy buenos resultados entre diputaciones ayuntamientos y entidades locales y que desde la usurpación por parte del gobierno vasco por parte de ura de la gestión del agua a los entes forales

la armonía la sintonía y el buen hacer que era un ejemplo de buena gestión decía la señora consejera

que ura iba a ser el instrumento ideal para garantizar fundamental de este proyecto de ley la eficacia cómo se equivocó la señora

señorías partiendo de una participación real de las instituciones decía como les decía la señora larrañaga se equivocó ura acabó ha acabado con la eficacia que era demostrada

con la inmediatez con la armonía con la competencia de las administraciones forales de los ayuntamientos y de los entes locales

larrañaga que ura será la única institución responsable del plan hidrológico de la gestión del dominio público de las obras de interés público aplicando eficacia participación coherencia y amplitud de competencias de nuestra comunidad la realidad después de once años ha demostrado que ni cercanía ni eficacia ni coherencia nada de esto se da hoy

en esta cámara residía la competencia para declarar las obras de interés general pero por mor de dicha ley de aguas esa competencia pasa al gobierno vasco ahora reside en ura

ni diputaciones ni entidades locales ni usuarios el gobierno exclusivamente esta usurpación de competencias nos ha aportado algún beneficio pues no lejos de aportar algún beneficio ha generado desequilibrio territorial de trato de atención a las necesidades básicas

retrasos de obras de veintidós años primer acuerdo dos mil cuatro convenio con la diputación foral de álava segundo acuerdo convenio dos mil ocho aquellas obras se han vuelto a retrasar en dos mil diecisiete para que lleguen

obras que eran necesarias en el dos mil cuatro pero de qué vamos dos mil cuatro que hay que recordar que teníamos unos superávit de ingresos del diez por ciento anuales

tenemos peor calidad de las masas de agua y un estado ecológico y algo muy grave acoso al administrado estamos en esa situación

me he fijado mucho en la enmienda que ha presentado el gobierno y el gobierno vasco considera que los fondos dedicados por el gobierno vasco a auxiliar

sus fondos proceden de las diputaciones forales eso para empezar y dicen que en la financiación de proyectos y abastecimiento de aguas deberá aplicarse en base a una serie de criterios de selección y condiciones previamente establecidos y aprobados

diez años de la ley y ese reglamento que dicen que van a hacer nunca lo han hecho porque no les interesa porque esa es la discrecionalidad del gobierno

y no lo van a hacer nunca y dicen el parlamento vasco considera que estas inversiones cofinanciadas por el gobierno vasco cofinanciadas no financiadas al cien por ciento por las diputaciones forales al cien por ciento

hay que optimizar el impacto de la inversión y su retorno social y ambiental

pero vamos a ver hasta que llegó ura qué pasaba qué pasaba hasta que llegó ura estaba todo desbaratado estaba todo descompuesto estaba todo desorganizado no como le he dicho había

atención trato respetuoso al administrado entidades locales y vecinos que hoy no se da que es una

y que va a haber que empezar a tomar cartas en el asunto no llamar y por favor

no habrá que pasar a otro estadio claro que sí y luego dicen optimizar yo como les decía

que ya el gasto solo optimizaría bastante nos dedicaría recursos para que las diputaciones ejerzan la función que siempre han

opinión y una manera de optimizar que dicen ustedes en su enmienda nosotros desde luego

la enmienda que se ha transado entre el grupo podemos y el grupo eh bildu corresponde a lo que tantas veces hemos dicho nosotros en esta cámara no es que estemos haciendo ningún quiebro es lo que tantas veces hemos dicho en tantas iniciativas a lo largo de nuestra trayectoria por lo tanto que no le sorprenda
nuestro apoyo a esa enmienda eskerrik asko

antes de replicar a los grupos tengo que decir que en la transacción que se ha pasado hay repetido dos puntos el tres y el cuatro

ha sido simplemente por las circunstancias de este pleno es cierto

usted dice que el gobierno no tiene competencia y nuestro grupo interpreta que eso no es del todo cierto si nosotros hablamos de cofinanciación

la ley de aguas le da al gobierno una competencia en la conservación de las masas de aguas y eso exige depurar las aguas residuales si no hubiera ninguna competencia

aunque sea y eso lo admito de segundo orden bien

es necesario tener unos criterios y unos principios y yo le insto a su gobierno a que los escriba que sea capaz

y entonces veremos si esos criterios son objetivos si se necesitan garantías de mantenimiento exíjanlas si necesitan una solvencia en cuanto a técnica o lo que sea exíjanla pongan los criterios y hagan la valoración correspondiente

actualmente puntúenla lo que digo es que necesitamos unos criterios y unos principios objetivos yo no he hablado ni de arbitrariedad

cuanto menos interpretables y creo que es así la oportunidad o la idoneidad o incluso el concepto del equilibrio territorial en este país teniendo como tiene a día de hoy el pnv el melón de la ley de aportaciones abierta pues vamos

y creo que si alguien puede hacer a día de hoy dentro del gobierno

son ustedes los socialistas y no el partido nacionalista vasco porque yo no sé si al señor arruabarrena

pero ha dicho que lo que hay que hacer es hacerlo sin mediación de técnicos no señor

si yo lo que quiero es que los criterios y los principios se apliquen por parte de los técnicos y técnicas y no por parte del estamento político cuando lo aplica el estamento político es cuando como usted dice

usted ha llegado a decir es injusto tratar a todos por igual

no tratar a todos por igual tratar a cada uno según quién sea y qué haga

que efectivamente es un consorcio solvente pero no puede ser que el consorcio de aguas bilbao bizkaia tenga convenios por valor de once millónes

precisamente si hay un consorcio que es más potente y que tiene una financiación asegurada sea por las vías que sean

es que el gobierno establezca unos criterios para hacer una especie de compensación territorial y no una especie de adjudicación a dedo de los recursos que luego no tiene un reflejo práctico

lo ha dicho la señora rojo es garantizar un adecuado estado ecológico y una adecuada calidad de las masas de agua y a día de hoy es

y no puede ser que sea el que reciba los menores recursos

de esto no quiero hacer una confrontación territorial es una mera constatación de la situación real a día de hoy del medio ambiente en araba y de sus ríos

bai gutxienez puntualizazio pare bat rojo anderea ha tenido un pequeño

delata algo que es interesante de fondo usted ha dicho que álava es la provincia más pequeña y álava no es la provincia más pequeña álava es la provincia más grande pero de menor población quiero decir que

grande y tenga tanto cauce y tanto río que cuidar hace que siendo la de menor población muchas veces se tenga menor músculo financiero

es venir a compensar esa carencia de músculo financiero que podía tener por lo tanto el detalle creo yo que es importante no confunda el tamaño con la población

sobre todo de presupuestos no me voy a enredar pero ya que usted lo viene haciendo ya

cuestiones usted como ha dicho bien desde los años dos mil ocho a dos mil doce que ura tuvo unos presupuestos para infraestructura hidráulica bastante

y después a partir de los presupuestos de dos mil trece dos mil catorce tuvo un recorte del cerca del cincuenta por ciento

presupuestos con esos recortes tan tremendos y a partir de ahí

gracias señora presidenta señora lópez de ocariz es verdad conocemos la posición que ha mantenido el partido popular respecto a este tema porque además usted ha sido una portavoz que ha traído muchas veces el tema de las infraestructuras hidráulicas en la provincia de álava a este pleno y decía

a mi grupo desde luego no le sorprende y ese a veces es el problema que no me sorprende cuál va a ser la actitud que va a mantener su grupo respecto a algunos asuntos pero quien le habla fue la portavoz de la ley de aguas llegué al parlamento y fue lo primero que cayó en mis manos y la ley de aguas

es verdad que votó en contra y lideró la posición contraria a toda la ley pero recordemos con quién pactó la señora esther martínez cuando hubo que decidir quiénes formaban parte de ese consejo el primer consejo

quitando a quienes habíamos aprobado y defendido la ley

que fue concretamente la portavoz del partido popular para sorpresa en aquel momento sí

sucedió porque no gustaba la ley pero gustaba estar donde se decidía aquello

el principio de todos los problemas de lo que tiene que ver con el agua obviamente usted

que el gobierno vasco y quienes lideran el departamento de medio ambiente no desconocen los entes de álava no se saben efectivamente que no solo es amvisa porque amvisa abarca el municipio

que es el ochenta por ciento de la población usted lo sabe porque sería ya no sorprendente

cómo no lo va a saber el departamento la palabra auxilio si alguien lo busca en el diccionario dice textualmente

pero quiero decir real academia de la lengua la definición es la que es y efectivamente ura acude en auxilio porque vuelvo a repetir que no es competencia suya otra cosa es que lo haga porque entiende que tiene que hacerlo porque va en beneficio del servicio que reciben los ciudadanos vascos

señor becerra usted hablaba de interpretaciones mire yo aquí no vengo a interpretar nada porque si empezamos a interpretar aquí todo lo que sucede

no sé si llegaríamos a algún acuerdo yo más que interpretaciones veo una cierta desconfianza y me preocupa que cuando se habla de los entes gestores a veces importa más quién está detrás del organigrama del ente gestor que qué es lo que realiza el ente gestor y yo

que detrás de muchos consorcios los lidera o los preside personas del partido nacionalista vasco pero es que mire la bancada

y no le van a repartir en este caso a los que tienen menos a veces no interpretamos nada es que yo creo que detrás de esto hay una cierta desconfianza que podemos acabar interpretando

en ese ente gestor y acabamos yendo en prejuicio del servicio como digo que deben recibir los ciudadanos vascos y hablaba usted de aquellos convenios que se firman y que efectivamente hay municipios afectados pero también hay que tener en cuenta

afecta a un porcentaje de población no comparable a otros

y eso no lo podemos negar por tanto efectivamente hay unas inversiones y hay unas partidas presupuestarias que maneja el consorcio de bilbao que obviamente no lo maneja

cuál es el porcentaje de población que le afecta a ese consorcio y luego señor otero decía usted que ura que es verdad pero discúlpeme en esto de pequeño o grande no voy a entrar en esa discusión y

pero usted decía que ura debiera de compensar la dificultad de un municipio como álava que es verdad que es más grande pero

insisto tenemos más de doscientos cincuenta entes gestores a diferencia de todos los demás y debe compensar

a dos mil veintiséis tendrá unas más de ciento setenta y cuatro obras

del estado de las infraestructuras y de la necesidad que tiene este territorio histórico para tener inversiones

de esos doscientos millónes de euros van a ser parte financiados por el gobierno vasco parte por la diputación foral de álava parte por los entes locales y setenta millónes el gobierno de españa quiero decir que todos conocemos el estado de la situación

y estamos todos implicando en solventar y como usted decía compensar la situación que vive el territorio histórico de álava frente a gipuzkoa y por lo tanto me parece y termino presidenta que en lo que tiene que ver con las infraestructuras hidráulicas y todo lo que tiene que ver con el abastecimiento y saneamiento el gobierno vasco tiene mucho que decir y lo ha dicho

pero teniendo en cuenta las competencias que tiene cada uno insisto auxilio es ayudar en caso de peligro o necesidad ni es caridad ni es nada más

de la que no dispone y entonces se hace pero vuelvo a insistir que no nos olvidemos de quiénes son las competencias de cada uno y es muy peligroso señor becerra depende qué criterios pongamos

acaben siendo los primeros perjudicados nada más muchas gracias eskerrik asko rojo

eskerrik asko no había señora lópez de ocariz un

mi intervención sino en explicar de qué estamos hablando en explicar nuestra postura

y en defenderla y en decir por qué no podemos apoyar

la transaccional que han firmado bildu y podemos lo que me ha quedado

creo que no las ha mencionado y son el nudo de la propuesta de eh bildu es decir ha hecho usted una intervención prejuiciosa sesgada porque como hablamos de ura

que le han hablado mal de ura como va de eso vamos a votarle en contra al gobierno esto es lo que yo saco en claro de su postura de hoy no tiene nada que ver en si el concurso público se ha de hacer prefijados si hay que marcar estos criterios en el decreto que es lo que estamos hablando hoy por tanto y luego le digo una segunda cosa si hace usted un alegato contra ura contra el reparto competencial sobre si las diputaciones funcionaban mejor cuando no existía ura que por cierto

la estructura una estructura similar ya existía previamente pero en todo caso si tenemos una ley de dos mil seis y ustedes son un grupo político que al menos funciona desde el dos mil seis

pero esto de que cada vez que se hable de ura vamos a votarle en contra al gobierno no es riguroso hablan ustedes de retrasos en obras mire yo en mi primera intervención quizá porque

en convencerle de que se abstuvieran al menos no lo he mencionado pero hombre de retrasos el partido popular sabe algo o sea si la mayor prioridad que tenemos es el alto nervión

de interés general desde el año dos mil uno ya sé que usted me va a decir que antes era competencia de euskadi que en no sé cuántos años no se hizo nada pero vamos a ser

y a la hora de lanzar la piedra por lo menos tener en cuenta toda la realidad la principal prioridad que tiene euskadi está en manos

del gobierno del estado más cositas

y por último señor becerra ha hecho usted un alegato así en plan romántico

mire si precisamente no tratara a todos por igual en este caso precisamente no es privilegiar a los grandes sino es beneficiar a los consorcios

si es que es materialmente imposible que un concejo de cuatrocientos habitantes con lo exigente que es

es que es materialmente imposible por muy comprometidos que estén los vecinos en el consorcio por muy de proximidad que sea por muchos vecinos que hagan allí juntas es imposible porque el nivel técnico que se exige es gigantesco y sí las diputaciones pueden ayudar

dos mil seis para entonces ya había un convenio de obras hidráulicas necesarias para álava especialmente y también para otros territorios pero ustedes negociaron puestos no negociaron financiación no negociaron

nada de eso negociaron están en el gobierno han negociado acuerdo de gobierno se

la que tenemos que hacer lo que ustedes han sido incapaces de poner en su acuerdo de gobierno no señora rojo todo no no mójense ustedes y pongan algo

para solucionar los problemas de los ciudadanos vienen aquí a solucionar sus problemas no los de los ciudadanos y en esas estamos señora rojo me decía que

usted y yo lo vimos en la comisión que desconocía plenamente que había consorcios en agua y cuando disertó un largo rato de lo conveniente que era un único consorcio para álava y fue

no tuvo respuesta no tuvo respuesta eso está en la hemeroteca de esta cámara por lo tanto señora rojo

son datos objetivos y señor arruabarrena me saca las obras del alto nervión

que lógicamente paralizó toda la gestión que ya lo sabía y se dedica año y medio a cultivar su ego ese es su modelo oiga

pues paralizadas señor arruabarrena esa es la realidad triste realidad que sufrimos los vascos y en esta ocasión los alaveses y toda la comunidad autónoma de euskadi

señorías bien volvemos sobre una materia sobre la que ya hemos hablado y se ha pronunciado también esta cámara y recordamos que el pleno

aprobó la proposición no de ley catorce barra dos mil dieciocho relativa al rechazo

o que estuvieran vinculadas a sus actuaciones con arreglo al siguiente texto decía el parlamento vasco manifiesta su rechazo a los homenajes públicos que se realicen a personas

la violencia como medio para conseguir fines políticos decía

esos homenajes eran contrarios a la defensa de los derechos humanos y suponían además una revictimización de las víctimas del terrorismo bien desde la aprobación de esta declaración se han seguido produciendo muchos recibimientos muchos actos de enaltecimiento y homenaje

en nuestras plazas en lugares públicos de distintas localidades de nuestra tierra y las principales asociaciones de víctimas han reiterado su repulsa su profunda preocupación por la impunidad

a las leyes además el uso de símbolos honorables el uso del aurresku de las ikurriñas de las makilak

pasillos flores ocupación del espacio público en una exaltación permanente del crimen y hemos de destacar

constante la presencia reiterada de menores de edad de niñas de niños de jóvenes en los actos de homenaje a los terroristas donde estos niños estas niñas jóvenes son utilizados para aplaudir para besar para abrazar para acompañar vitorear una de las expresiones de radicalidad más rechazables e incompatibles con la educación en valores de respeto a los derechos humanos esta es una cuestión muy grave esta utilización de los menores en los actos

es muy grave y se repite constantemente

de estos actos de recibimiento y homenaje es una cuestión que además bien podría analizar en un informe especial el ararteko es decir esa utilización de los niños y de los jóvenes en actos de homenaje a criminales

muy esenciales muy importantes en este país por parte de la oficina del ararteko creo que estamos ante un caso de vulneración de los derechos humanos de los derechos del menor muy grave que yo le aconsejo desde aquí al señor comisionado del parlamento analice si le parece oportuno bien hemos alcanzado un acuerdo rechazando de nuevo los actos de recibimiento y homenaje a los miembros de eta que se celebren en nuestras calles y plazas lo hemos alcanzado se votará

cámara y desde luego del avance por los valores

que algunos defendemos en esta cámara cuando se presentó la

de julio agosto se desarrollaban en ese momento numerosos actos de homenaje

aquí en vitoria después en otros lugares como errenteria oíamos apellidos

es decir asesinos secuestradores

del terrorismo callejero una colección de criminales siendo

el observatorio de la radicalización de covite ha documentado este mismo año dos mil diecinueve ochenta y uno

además de los homenajes hay muchas otras expresiones pancartas actos mediante pintadas actos donde se ensalza a esos etarras a fallecidos es decir ahí están esos actos de todos esos actos del dos mil diecinueve

a los que se suman más de sesenta del dos mil dieciocho es decir desde que se aprobó

ha habido más de ochenta actos de

y eso desde que se aprobó por eso mismo es bueno reiterar ese compromiso de esta cámara con la defensa de los derechos humanos y con el rechazo

expresión de recuerdo terrorista y desde luego ahí está con los homenajes a los terroristas excarcelados la larga e infame sombra de eta vuelve a oscurecer el presente del país vasco tratan de convertir su derrota

por eso son especialmente significativas las palabras de delegado del gobierno en el país vasco jesús loza al afirmar reciente entrevista en verano en un medio de comunicación lo siguiente vistos los últimos ongi etorri hay opción decía el delegado de que a medio plazo rebrote el terrorismo

grave afirmación es decir y nadie puede decir que el señor loza no sea un experto

decía loza también hay que acudir a la vía administrativa poner las medidas para evitar que los homenajes se produzcan

instrumentos legales existen y ahí se apelaba sin duda al gobierno vasco y a su responsabilidad en relación con neutralizar esas expresiones de radicalidad

y según la ley vasca de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo de dos mil ocho las autoridades deben prevenir y evitar públicos que humillen a las víctimas y eso lo debe hacer desde luego

se lo demandamos en esa cultura del odio que surge del entorno de eta y de su proyecto político para el país

se instala toda esta expresión radical de los homenajes

es la cultura del odio ese odio que se transmite

en los homenajes en niños y niñas que son utilizados en los mismos bien hemos alcanzado un acuerdo en relación con esta cuestión y firmado tres puntos que dicen lo siguiente el parlamento vasco rechaza de nuevo los actos de reconocimiento con ostentación

por sensibilidad hacia las víctimas y al dolor de sus familias por respeto a la memoria crítica

y en una dificultad añadida de la construcción de la convivencia democrática entronca esto con lo que yo comentaba antes esto nos aleja de la convivencia estos actos de homenaje de enaltecimiento no hay nada más claro antes lo hacía el terrorismo de eta ahora son estos homenajes estas expresiones

el parlamento vasco reitera a los poderes públicos competentes la necesidad de garantizar las políticas de reconocimiento verdad justicia y reparación de vidas a las víctimas del terrorismo y de vulneración de derechos humanos eliminando los agravios sufridos y los que pudieran provocárseles esto

así como adoptando las medidas que eviten su ofensa humillación y

siempre décimos nosotros las víctimas en el frontispicio de la democracia las víctimas del terrorismo en este caso las víctimas de eta a las que nos referimos en esta iniciativa y para finalizar el parlamento vasco hace un llamamiento a las instituciones públicas

en relación con el cumplimiento de las leyes en relación con las obligaciones que tienen a los partidos políticos y a los agentes sociales

elemento clave elemento que ha estado siempre en el discurso de la exigencia

como recurso para la imposición totalitaria de proyectos políticos

totalitario que se ha querido construir lamentablemente para ellos ha fracasado

y se rechaza tanto en el pasado como en el presente como en el futuro donde eta todavía

hemos alcanzado este acuerdo para seguir denunciando esa situación insostenible y es fruto de la unión de los demócratas en ese a la radicalidad al odio de los homenajes de eta y de sus miembros se constata que si antes era la violencia terrorista de eta ahora es la radicalidad y la falta de deslegitimación del terrorismo

país vasco de la convivencia en ese sentido ese ha sido nuestro esfuerzo

iniciativa que hemos firmado con el grupo nacionalistas vascos con el grupo socialista con el grupo elkarrekin podemos agradezco al señor iturrate al señor prieto y al señor becerra

recuerdo que nuestra iniciativa era exigente en relación con

a través de nuestras iniciativas considerábamos que en ese sentido el haber alcanzado un acuerdo de estas características entroncaba

que alcanzamos en febrero del dos mil dieciocho en aquel momento y que la exigencia de esta cámara se proyecta hacia el entorno de eta de una manera contundente muchas gracias

egun on berriro ere hoy debatimos una proposición no de ley del partido popular sobre los homenajes a

no es un debate nuevo es un debate que ya tuvimos en febrero de dos mil dieciocho y que terminó con un acuerdo

partido socialista y nuestro grupo donde se contra los homenajes debido al sufrimiento que provocan en las víctimas gaur

iraunkorraren bila como sociedad la sociedad vasca creo que tenemos muy claro el rechazo a los homenajes a todos los homenajes hoy rechazamos los homenajes a miembros de eta como nuestro grupo también rechazó en su momento

todos los homenajes porque todos ellos revictimizan a las víctimas y porque todos ellos ensalzan un pasado violento y una violencia injustificada y porque también y aquí quiero utilizar unas palabras del foro social permanente son un elemento

tanto la construcción de la convivencia como los consensos sobre las personas que todavía están presas la pregunta que me hago en este debate hoy es si es suficiente con que nuestra sociedad rechace los homenajes si es suficiente con ese debate político y con repetir ese debate político y con repetir los resultados de hace un año y si no deberíamos de ir más allá y si para ello no necesitaríamos sustituir el debate político por un debate ético

hoy vendría a decir que los familiares de una persona presa tienen derecho a recibirla a su salida de la cárcel

indebidamente de sus familias más allá de lo que exige la ley si ha estado alejada debido a la dispersión pero ese mismo debate ético nos dice que ni los familiares ni los grupos políticos o sociales organizados mucho menos los grupos políticos y sociales organizados tienen ningún derecho a exaltar la figura de esa persona y mucho menos sus acciones o su pasado

y aún menos tengo que decirlo en lugares públicos ante cientos de personas porque eso está provocando un sufrimiento está revictimizando a unas víctimas que en su momento ya tuvieron que sufrir las consecuencias de la violencia ejercida por esas personas

por lo tanto esos comportamientos no son admisibles ni desde el punto de vista ético ni tampoco desde el punto de vista político nos alegra

si bien no vamos más allá del rechazo al menos hayamos conseguido dejar fuera de las medidas que tenemos que adoptar las medidas policiales

eficaces ni tienen cabida en esta cuestión aquí lo que nos tiene que llevar es a ver cómo adoptamos medidas éticas en este país medidas éticas y no policiales para acabar

no basta con que rechacemos los homenajes es necesario pero no es suficiente nuestro grupo estará con la mano abierta para dar pasos éticos tanto con quienes lo rechazamos como con quienes no lo hacen

una convivencia estable y democrática para eso tenemos que aplicar no solamente

debates sobre cómo poner la ética en el centro de la actuación política de cada uno de los grupos que estamos aquí nada más gracias eskerrik asko becerra jauna

presidenta señorías los homenajes públicos a miembros de la banda terrorista eta que han cumplido condena por asesinar y extorsionar a demócratas a ciudadanos

solo tiene una intención tratar de manera heroica a quienes ejecutaron esos delitos en estos actos en los que participan activamente cargos públicos y políticos pertenecientes

el agradecimiento por los servicios prestados y el reconocimiento a su tarea los homenajes se han convertido en una más de las expresiones

brindan a estas personas y pretenden en lo político alcanzar una forma de blanquear el terror insinuando que para él hubo una justificación los homenajes si algo expresan

y al fanatismo y el desprecio a los derechos humanos

la distancia de un sector de la ciudadanía vasca con la democracia

y de convivencia expresan el déficit democrático acumulado durante décadas en ese sector de la ciudadanía y su resistencia a recorrerlo tal y como la inmensa mayoría de la ciudadanía demanda

son un intento de humillación son actos de chulería para recordar que mientras unos están en las tumbas otros se sienten satisfechos de que así ocurriera y la mejor forma de manifestarlo es mediante una fiesta pública

bajeza humana cobardía merece un rechazo unánime de cualquier institución democrática merece hoy por tanto el rechazo más radical de este parlamento los homenajes se han convertido en un modo de exaltación

son una alarmante señal de residuos vivos de intolerancia y fanatismo de un sector de la sociedad que muestra su resistencia a convivir democráticamente y a asumir el daño causado los homenajes demuestran el doble juego de una parte de la representación política de este país demuestran que en buena medida

está impostado y cualquier camino para edulcorarlo es su oportunidad

a quien mataba a personas indefensas a quien mataba al que no estaba a favor de la independencia solo produce vergüenza a una sociedad vasca que quiere vivir en paz y libertad y a la que los fanáticos obligan

a revivir lo peor de su pasado reciente quienes organizan actúan defienden o encubren los homenajes solo logran sumar rechazos y refrescar la memoria en euskadi y fuera de euskadi de la peor imagen del país vasco con los homenajes no gana nadie

pero lamentablemente esta es la aportación que algunos hacen al país que tanto dicen querer en una sociedad democrática y la nuestra lo es la más alta expresión de ética la más alta expresión de evolución es la no violencia quienes artificialmente la reviven

de esa ética muchos ciudadanos y ciudadanas la gran mayoría se preguntan qué hay que celebrar públicamente

con quienes asesinaron con quienes expandieron durante décadas el miedo

que no existe respuesta posible a esta pregunta una pregunta que se repite cada poco tiempo porque el último homenaje no es un hecho aislado el último de otros muchos que se han celebrado los homenajes se han convertido

hacia quienes fueron sus víctimas en una carencia de imaginación en una actitud que muestra ausencia total de inteligencia un odio que expresa la cólera de sus protagonistas activos y pasivos la venganza de la cobardía por quienes tienen aversión a la democracia un odio perpetrado a aprovechar todas las ocasiones para perjudicar a los demás y muy especialmente a las víctimas que volvamos a hablar en este parlamento de los homenajes a quienes salen de la cárcel por haber cometido actos de terror certifica las resistencias de este sector

los homenajes sus protagonistas activos y pasivos consiguen con este comportamiento dificultar la reparación del daño causado a las víctimas

retrasar la necesaria convivencia en el país vasco aumentar los temores sobre la reaparición de la intimidación y la violencia a la extrema derecha este conjunto de barbaridades merece un rechazo contundente de este parlamento y hoy sus protagonistas se lo van a llevar

reunir al conjunto de los grupos de esta cámara y que en mi opinión aunque en aras a la unidad ha sido posible hasta se queda corta

a la que estamos sometidos es absolutamente intolerable es una indecencia de una magnitud extraordinaria que solamente tiene

que no es ni la política ni la judicial ni tampoco la policial es que los autores de los homenajes
dejen de hacerlos eskerrik asko prieto jauna

y tan difícil sin embargo de asumir para algunos en este país y esa es la auténtica clave de bóveda de la construcción de nuestra convivencia actual y futura

va a ser muy complicado avanzar en proyectos de mayor dimensión y calado homenajear ensalzar o exhibir públicamente a personas que han sido miembros de eta que utilizaron o justificaron la violencia como medio para obtener finen políticos absolutamente rechazable y avergüenza cualquier sociedad decente y cuando digo esto me refiero también o sirve también para los homenajes

o a cualquier expresión de exaltación del fascismo de la violencia o del terrorismo

y es que a la inmensa mayoría de esta sociedad le duele que una parte de sus representantes institucionales no sea capaz de compartir una idea tan clara tan básica para la convivencia

no se pueden calificar de ninguna manera como un ejercicio del derecho al abrazo nadie está negando por lo menos nosotros no

su alegría cuando estas vuelvan a casa después de haber cumplido su condena nadie niega el derecho al abrazo y a que le faciliten su reincorporación a la vida cotidiana en este sentido señor barrio me gustaría señalar al hilo de un comentario que usted hacía

y que los derechos de reunión y de expresión como reiteradamente

y con protección constitucional y por lo tanto ni una ley autonómica como la ley de víctimas del terrorismo puede limitar y de hecho

pero insisto no queremos negar el derecho al abrazo pero es que no estamos hablando de eso no es eso lo que ocurrió

lo que se organizó no fue un abrazo se organizó un acto de bienvenida en plena calle se organizó un acto con todos los elementos de una celebración banderas bengalas carteles irrintzis eslóganes música y aurresku de honor se organizó un homenaje público a la vista de todo un pueblo un acto que se convirtió en una exaltación a las personas recibidas

y aún diría más el homenaje público no fue una consecuencia indeseada del ejercicio del derecho al abrazo sino que el acto se concibió

el objetivo era hacer ostentación pública y política del recibimiento y de la trayectoria de las personas recibidas porque las cosas se pueden hacer así o de otra manera y de hecho ha habido otras ocasiones y otras formas de recibir a la gente

esa y desgraciadamente estas actitudes no aportan nada a la construcción de una memoria crítica del pasado no aportan nada al reconocimiento del daño injusto causado nada a la construcción de una sociedad basada en el respeto a los derechos humanos estas actitudes solo producen un dolor añadido a las víctimas

en su dolor y en el dolor de sus familias es el momento y ahora tenemos tienen algunos diría yo la oportunidad de reconocer que con actos así

hori da bidea biktimek merezi duten begirunea jaso dezaten en este sentido destaco y comparto las consideraciones que el foro social permanente ocasión de los ongietorriak organizados este verano destaco y comparto esa idea del foro cuando dice la sociedad vasca no acepta que se sigan añadiendo situaciones de dolor a todo el sufrimiento ya acumulado

destaco y comparto su opinión que desde el respeto a los familiares y allegados a alegrarse por su excarcelación

se pueden desarrollar en espacios cerrados destaco y comparto con ellos el respeto absoluto al dolor de todas las víctimas y su derecho a la verdad la justicia y la reparación

ese es el camino y no es tan complicado no añadir dolor a las víctimas desarrollar los actos en espacios cerrados

sabemos que la iniciativa que nos trae el pp no da puntada sin hilo y el silogismo lógico que emplea es son homenajes

actúe el pp exige al gobierno concretamente al departamento de seguridad que actúe les interpela a ustedes señores del pnv y psoe para la incontinuidad lógica con la que ya se aprobó el año pasado ahora

si antes se tacharon entonces de homenajes ahora

que impidan estos actos que carguen que disuelvan que detengan que pongan a disposición de la audiencia nacional y ya allí sus jueces ya dictarán sentencia de las misma manera que el señor barrio dicta sentencia en base al tipo penal de enaltecimiento del artículo quinientos setenta y ocho del código penal en su

de su iniciativa tipifica así estos actos por entrañar descrédito menosprecio o humillación

becerra que no había una solución policial

actos pero les han acogido en su enmienda transaccional y el propio el señor barrio ha vuelto a dejarlo claro en esta cuál es la intención que persiguen por medio de esta iniciativa eta nik

ateratzeko asmoz decía julián ríos jurista y estudioso en el tema del sistema penitenciario

que la pena que cumple mucho más que su relación con la justicia o el sometimiento al sistema penitenciario que ha padecido

algo más antes de entrar en prisión es algo más durante el cumplimiento de condena y es algo más después de consumirla

y convertirla en perpetrador eterno y para siempre y constato que tiene más facetas en la vida y por ellas se acerca

desde una proximidad política no lo niego pero también desde una proximidad humana personal a quien ahora su condición de conciudadano de convecino estos actos son expresiones de acogida a una persona en el pueblo a una persona que ya ha cumplido su condena no se pueden vincular con hechos de enaltecimiento glorificación o apología de organizaciones o actuaciones que afortunadamente ya no no es real no viene con el principio de realidad

ere euren azalean sufritzen duten politika penitentziarioa sin duda revertir la política penitenciaria de excepción conllevaría cambiar el modo en el que el preso accede a la

si en vez de cumplir hasta el último día de pena en una prisión a cientos de kilómetros

está en su entorno si opta como el resto de presos a salir de prisión con permisos

y sin una hora h no existirían los

consideramos que precisamente es esto lo que tenemos que enfrentar una salida

progresiva que es lo que sucede además con el resto de los presos que normalice

y es esto precisamente lo que se está negando ustedes sin duda señores del pp y tal vez algunos de los que han acogido

que les dejen a los presos en la puerta de la cárcel de algeciras

y fueran allí abandonados no encuentren a nadie que les recoja

cuando ya estén en su pueblo tengan un encaje imposible en su sociedad en su entorno quisieran que estén eternamente marginados sin esperanza

ni ningún arraigo nosotros no queremos que esto suceda

expreso sin un horizonte de arraigo social sin una esperanza de futuro es foco de otros problemas que seguro nadie quiere ustedes

en un momento en que además entendemos que la mayoría social precisamente pretende o prefiere vaciar las cárceles y ustedes proponen que se vuelvan a llenar esta vez

estaba rechazando las denuncias que se estaban presentando por estos actos ahora tenemos que decir que las están acogiendo que se han abierto procedimientos que se han abierto diligencias y que ya se ha tomado declaración a un amigo de un preso por participar en un ongietorri

desde luego agradecer a todos al

la firma de esta iniciativa por parte de todos pero decirle al señor becerra que sí que desde luego tiene razón las medidas éticas son importantes pero en

las medidas jurídicas están ahí y se tienen que utilizar en caso de incumplimiento el código penal en caso de incumplimiento de la ley

del terrorismo se tiene que aplicar y para eso están las leyes nosotros entendemos que sí que

otro tipo de medidas otro tipo de debates pero que no hay que descartar ni mucho menos y es lo que nosotros exigimos y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo

esos actos de recibimiento de exaltación de homenaje a eta y a lo que representa volviendo a lo que ha comentado el

hombre hoy es un día malo para usted y para lo que usted representa y yo me alegro

está bien claro que con su discurso usted lo que trata es de manipular la realidad

no hay homenajes de que no hay recibimientos

pues debe ser usted el único que la percibe así vamos a ver la mayoría la inmensa mayoría de la sociedad

casi todos los partidos políticos el delegado de gobierno

la inmensa mayoría de las editoriales de los medios de comunicación vascos españoles el propio lehendakari

todas estas personas lo han entendido como lo que son como homenajes a eta como recibimientos y que esas expresiones son malas para la sociedad esas expresiones nos alejan de la convivencia que hay que rechazarlos y eso lo hemos visto y eso lo hemos oído

labor de conducción de lo que es la idea el pensamiento de lo que rodeaba a eta públicamente

de lo que no es interpretable es decir por eso mismo la sociedad los partidos el lehendakari el delegado del gobierno hemos oído lo que hemos oído vuelvo a poner de manifiesto lo que el delegado del gobierno manifestaba en julio o en agosto en relación con los homenajes

hacía decía que son la antesala de un rebrote o pueden serlo que hay riesgo de un rebrote de la violencia y del terrorismo

no se lo inventa el partido popular y trae el partido popular que usted también se convierte permanentemente en el intérprete de lo que nosotros podemos traer o decir o cuáles son nuestras

no hemos convencido de nada a la cámara hemos llegado a un acuerdo y por eso le decía yo a usted que es un mal día para usted y para su grupo y que yo me alegro

esas reflexiones y el delegado del gobierno es el que ha dicho que hay que adoptar medidas administrativas para el cumplimiento de las leyes que las hay pues eso

y lo que desde luego cada día la interpretación que usted hace se aleja mucho más de esa interpretación que hace ese conjunto de la sociedad y

ahora de la expresión de la identificación de esos actos de exaltación de esos recibimientos de esos homenajes ahora la culpa va a ser de los medios de comunicación porque hablan de ellos porque los ponen en los medios de comunicación para que los demás nos enteremos porque hablan de que se ha recibido

o al asesino de un montón de policías de guardias civiles o de concejales

apoyan jalean participan en los homenajes a los miembros de eta es decir todo el mundo tiene

que las medidas policiales y judiciales están fuera de lugar no es que lo diga nuestro grupo sino que ya lo han dicho los propios jueces

por mucho que pudieran ser deseables para ustedes en la realidad no son posibles si en esta transacción hubiera habido medidas judiciales o policiales nuestro grupo no hubiera estado en la firma no hubiera estado en la firma porque yo repito aquí que lo que tenemos que aplicar son consideraciones éticas nuestro grupo no vino

sino para tratar de aportar una nueva voz no más autorizada por supuesto pero una nueva voz

usted señor arzuaga nos ha querido llevar a un debate

homenajes y el debate no está ahí tampoco está en cuántas personas se juntan tampoco está en si se juntan en un espacio público o no sino en para qué se juntan esas personas y

cuál es el resultado respeto de las víctimas de que se junten esas personas

evidentemente nuestro grupo tiene una posición ética y el suyo tiene otra y si entramos en ese debate ético podríamos empezar a llegar a conclusiones a nuestro grupo e imagino que al suyo nunca nos gustaron los homenajes a los gal nunca nos gustaron

su portavoz el señor otegi decía en dos mil uno en este pleno decía refiriéndose a los socialistas imagino

el señor rafael vera y el señor barrionuevo eran ciudadanos dignos del máximo de los respetos lo dijeron hace dieciocho años no eran ciudadanos dignos del máximo de los respetos

y lo defiende éticamente entonces la cuestión es si aplicamos diferentes consideraciones éticas usted dice

el propio foro social permanente ha dicho en su nota de prensa del treinta y uno de julio que los homenajes ponen en peligro los consensos existentes en la cuestión de las personas presas

lo que tenemos que mirar es el resultado que consiguen con esos homenajes no mirar las cuestiones terminológicas

no aceptan el digamos suelo ético que se ha establecido en esta cámara no aceptan que la violencia fue injusta no aceptan así con estas palabras que matar estuvo mal pero sí han aceptado y han dicho lamentamos el daño causado a las víctimas entonces yo les pregunto aquí y ahora lamentan ustedes el daño a las víctimas causado por los homenajes de este verano y con esa respuesta
veremos si tenemos una base o no tenemos una base gracias eskerrik asko becerra jauna

presidenta señorías lo peor de este debate en relación con el anterior cuando se trató también en este parlamento se hayan sucedido una serie de homenajes que también lo es que es gravísimo sino lo peor es que una vez más bildu vuelve a rechazar

una convivencia entre todos para poder establecer una ética entre todos para reconocer que matar fue

en cierto modo con las víctimas el daño causado el problema es que cada vez que se produce una oportunidad en este parlamento para poder tratar de sumar para intentar que se pase página a ese periodo

bildu lo que hace es dar pasos hacia atrás es

más en la esquina más en el extremo esto no nos llena de sorpresa pero sí nos llena de indignación no nos causa sorpresa

en los que permanentemente se trata de deslegitimar a la democracia y a los instrumentos de la democracia son muchas las intervenciones de bildu en esta cámara en la que ante cualquier actuación de la ertzaintza se le pretende criminalizar

en la que ante cualquier manifestación en relación a los terroristas de eta se les da la consideración de presos políticos en las que

se pretende establecer una relación de heroicidad en lo que hicieron o que hubo alguna causa noble que les motivó y que les llevó a ejercerlo

la enorme distancia que mantiene bildu que mantiene sortu con la democracia con las convicciones democráticas con la ética con la

con los valores que tienen que presidir a cualquier formación política y a cualquier institución democrática esto es lo realmente grave de esta situación

de las palabras del portavoz que una vez más trata de hacer esos discursos alambicados con infinidad de palabras y palabrejas

que están vacías que lo único que hace es

unanimidad que hay en el conjunto de los demócratas de esta cámara y ser un poquito más cauto y entonces hacer una especie de tesis sobre lo que es o no es un homenaje este es el juego que en realidad o no esconde porque a nadie se le pasa por alto esa

para homologarse a la democracia para tener un comportamiento democrático para tener un comportamiento ético para tratar de que en el país vasco de una vez por todas pasemos página de tanto horror en la que algunos de ustedes fueron importantes protagonistas y todavía parece que

señor arzuaga es que no todo lo moralmente reprobable es delito

desde la ética y la moral pública que existe y que cualquier sociedad tiene que tener una mínima ética pública compartida

el autobús de hazte oír paseándose por las calles del estado incluso de euskadi diciendo que los niños tienen pene y las niñas

la realidad y los derechos de ciertas personas es en mi opinión una indecencia y avergüenza a la mayoría de esta sociedad empezando por ustedes que por cierto en este caso sí piden a la autoridad que prohíba al autobús

por las calles de euskadi y exigen al gobierno vasco que prohíba al autobús que funcione

es indecente y avergüenza según usted en los homenajes en lo que hemos visto en esos pasillos con bengalas

se grita de todo no se homenajea no se exalta una historia

hasta dónde se puede permitir el abrazo hasta dónde puede llegar cuánto puede ser de apretado o no

que en vez de las dos personas que estaban haciendo aquel

fuese por ejemplo el falso shaolín quien estuviese haciéndolo y sinceramente respóndase si usted estaría manteniendo la misma postura

kontzeptuala señor prieto usted efectivamente no es de

usted es más de despedidas como aquella ante la cárcel de guadalajara en la que el psoe

a barrionuevo y vera encarcelados por sus responsabilidades de terrorismo de estado y por vinculación al gal

estas no tenían derecho a sentirse humilladas y el señor becerra mencionaba el tema pero hay una diferencia y la diferencia es que estos cumplieron apenas unos meses de cárcel se les dotó de absoluta impunidad

les dio el indulto y hoy en día el señor vera todavía sigue

reconociendo cuál fue su implicación en el terrorismo de estado manipulo la realidad me dice el señor barrio

apoyarme en el mandato constitucional el preso tiene derecho a su reintegración social a su resocialización al principio rector de política

de la condena y tampoco me gusta pero no manipularé tanto la realidad cuando la audiencia nacional su audiencia nacional todavía pábulo a sus intereses de exaltación o de considerar que hay enaltecimiento en este tipo de iniciativas me preocupa mucho la presencia de niños

en aquella especulación grotesca que hacía el señor loza diciendo que era caldo

pero no se preocupa tanto por estos niños cuando tienen que coger la mochila cada fin de semana para recorrer cientos de kilómetros para poder visitar

queridos no se preocupan por el agravio que les es el sufrimiento de tener que hacer una visita en estas condiciones y a mí sí que me preocupa la espada de damocles que pende sobre ellos por medio de la dispersión y por la posibilidad además de que tenga un desenlace fatal ya sé que a usted esto le da exactamente efectivamente señores del pp porque ustedes no tienen problemas con los homenajes los perpetradores de graves vulneraciones de derechos humanos bajo su responsabilidad

ustedes les otorgaron indultos les recompensaron

y les ascendieron es más los trajeron aquí el día que

una ley de víctimas y les pusieron en frente de sus víctimas para negarles su mera existencia siga usted
lecciones sobre respeto a las víctimas eskerrik asko arzuaga jauna

encomiable labor de las personas que cada día defienden de manera pacífica los derechos humanos y de aquellos que se ven obligados a abandonar sus territorios y modos de vida como medida de protección asimismo compartimos su incondicional apuesta por la paz y el apoyo a la labor realizada por la justicia especial para la paz la comisión de la verdad y la aplicación integral de los acuerdos de paz lau valoramos

para perseguir cualquier delito cometido contra personas defensoras de derechos humanos

bost instamos a las instituciones a implementar mecanismos de prevención y protección colectiva